alderantziz akatsean sakondu da aquel seis de junio este parlamento instaba entre otras cosas a la dirección de e i te be a que cualquier medida que pudiera afectar a los puestos de trabajo

hoy veintiséis de noviembre de dos mil quince podemos constatar que el ere que se impuso en eusko irratia y que afectó a radio vitoria no fue ni mucho menos consensuado por el contrario inauguró una fase de conflictividad social

vasca que aún hoy sigue vigente porque aquellas medidas afectaron a la plantilla de radio vitoria reduciendo el número de trabajadores y trabajadoras un veinte por ciento en dos años pero esas medidas también han dañado el desempeño profesional de quienes continúan trabajando en radio vitoria

para cubrir las mismas necesidades conclusión se dejan de hacer cosas que deberían hacerse y otras se realizan con menos dedicación todo esto

que solo es paliado por el sobre esfuerzo de la plantilla y esto es un paso

de la emisora decana de álava para nosotros los socialistas vascos y por supuesto para los socialistas alaveses

tiene un carácter estructural e histórico nuestra idea nuestro concepto de radio vitoria es diametralmente opuesto al de la actual dirección del ente público en mi opinión

mostrando hacia nuestra emisora tiene que ver con un desconocimiento y o un desprecio histórico hacia la labor y el significado

me van a permitir sus señorías que haga un poco de historia porque creo que vendrá bien para contextualizar el debate en sus justos términos con la recuperación del autogobierno el gobierno vasco

una cobertura de medios de información que respondieran a sus objetivos de comunicación la compra de medios escritos no se llevaba no era oportuna bastaba con lo que el partido que apoyaba al gobierno adquirir o crear y posteriormente competir en ese difícil mercado la vista del gobierno se fijaba entonces en los medios audiovisuales en el caso de la televisión por razones obvias no había más remedio que montar una por cierto como dijo uno de sus primeros directores para nacionalistas hecha por nacionalistas en el caso de las radios era diferente

básicamente podemos decir que el mercado de nuestras radios sigue teniendo una gran fuerza hoy mismo en ese ámbito local consciente de todo esto el gobierno vasco

hacerse con tres radios localizadas en las capitales de los territorios históricos para estructurar su propia red de radios radios públicas locales radio bilbao y radio san sebastián eran propiedad de la cadena ser que no tenía entre sus planes desprenderse de ellas y que en cualquier caso hubieran tenido un precio inalcanzable radio vitoria era otra cosa propiedad de la entonces caja municipal de vitoria

además a un precio asequible es a partir de este momento

públicas vascas después se crearon euskadi irratia en euskera y radio euskadi en castellano para completar el entramado de radios públicas es una una idea extendida a nivel popular y corroborada por las audiencia

eusko irratia tiene más presencia en gipuzkoa y que la radio de vitoria y de álava es radio vitoria volvemos a lo mismo las radios responden a criterios locales

la que más consolidado tenga este carácter señorías

es que en los medios de e i te be se menosprecia a este territorio no hay más que presenciar un partido de pelota en las fiestas de la blanca para escuchar repetidamente el slogan etb bilboko telebista

de la misma yo creo que es una realidad que en la radio televisión pública vasca las noticias que se refieren a álava se relegan por detrás

y no me estoy refiriendo solo a las noticias deportivas donde alavés y baskonia no ocupan el espacio que merecen me estoy acordando ahora mismo de una noticia emitida en etb sobre una pasada vendimia en la que la información no se emitió desde rioja alavesa como hubiera sido lógico dada la importancia de esta en la comarca

que sin quitar merito al vino que allí se produce no creo que pueda considerarse ni de lejos una zona vitivinícola de la importancia de la comarca alavesa

cuando toda la ciudadanía alavesa contribuye con sus impuestos a sostener el medio público

es más necesario gastar en corresponsalías redes emisiones o personal destinado a informar

por eso exigimos que a radio vitoria se destine la parte presupuestaria y los medios técnicos y humanos suficientes para que continúe su labor informativa dirigida a quienes pagan estos impuestos esto no es un capricho responde al criterio de que la radio pública

ante la sociedad alavesa fundamentalmente es la única que ofrece una programación generalista y local el éxito de la audiencia de vitoria se debe a ese criterio es decir a la cercanía y la empatía con vitoria y álava

una radio con la que se identifican la mayoría de alaveses y alavesas un medio

de vitoria y álava y que se incluye como un elemento más de su propia autoestima

y la capital de euskadi merecen tener un canal propio y público de información no cabe la menor duda radio vitoria es un canal de información local generalista y público que requiere los medios para seguir siendo está también perfectamente demostrado

público de ámbito autonómico no se cubre ese espacio insisto es necesario reforzar radio vitoria y no desmantelarla como parece que pretende la actual dirección de e i te be

en dos mil trece se comenzó a recortar plantilla y a pesar del posicionamiento mayoritario de esta cámara están profundizando en ese recorte

lo voy a decir bien claro los socialistas alaveses y vascos estamos convencidos

absorban a radio vitoria la estrategia es bien clara en estos dos años y medio hay en radio vitoria un veinte por ciento menos de plantilla además

a trabajar para radio euskadi salvando las conexiones para informativos y programas nocturnos el resto de las seis de la mañana a las nueve de la noche

este servicio de información y entretenimiento de carácter público aparte de la información programas producidos por la propia radio y que estén conectados con la realidad alavesa los propios trabajadores y trabajadoras de radio vitoria denuncian por ejemplo que la información cultural ha quedado huérfana porque el profesional especializado en este tema

en principio en dos mil trece se tomó una medida que fue el antecedente del ere que vendría después la no renovación de los contratos de varios profesionales con larga experiencia en radio vitoria fue

parecía una decisión aislada pero se han demostrado que obedecía a una estrategia perfectamente planificada

por ejemplo de ocho a catorce horas entre las ocho y las catorce horas y conectar después con radio euskadi menos programación menos producción propia menos calidad en la oferta este es el futuro que le espera a radio vitoria

porque lo que pretende la dirección de e i te be es relativizar la función de la radio alavesa e intentar demostrar su inviabilidad y a su plantilla no lo quedará otra que integrarse en eusko irratia y radio vitoria o irse a la calle

y las profesionales personas con una dilatada experiencia que dejaron su clara posición

sinceramente creemos que vitoria y álava no se merecen esto que los y las profesionales

hacen posible radio vitoria deberían ser estimulados por la dirección y no abandonados por esta

para apuntalar radio vitoria para que se le dote de unos medios presupuestarios humanos suficientes para que tanto la información como el entretenimiento que produce sigan teniendo

de profesionalidad de cercanía con su entorno que le ha caracterizado en estos ochenta y uno años de existencia hemos traído al parlamento este debate porque seguimos creyendo en la necesidad de que vitoria y álava cuenten con un servicio público de información adecuado a su realidad

que inspiraron la ley de creación del ente radio televisión vasca exigimos a la dirección de e i te be que cumpla con los mandatos emanados de este parlamento con todos pero en este caso en lo referente a la definición de la plantilla estructural que se asegure la continuidad de radio vitoria en los términos expresados

que se negocie con los trabajadores de la radio esto es lo que queda expresado en la enmienda de transacción que hemos firmado los socialistas con eh bildu y a la cual se ha sumado también el grupo del pnv

creo que los socialistas damos muestras cada día de la importancia que damos a los acuerdos y cuando estos son posibles

por eso pensamos que la aceptación de esta resolución

nacionalista la tomamos como una rectificación de lo que está haciendo la dirección de e i te be en radio vitoria y en el conjunto del ente la tomamos como un cambio obligado por su incapacidad para solucionar el problema laboral y de gestión que tiene problema

con la manifestación de los trabajadores y trabajadoras de radio vitoria ante este parlamento espero que la adhesión del partido

del único partido que apoya en esta cámara a la dirección de e i te be suponga un cambio de la actitud y rumbo que esa dirección esta manteniendo espero que la suma

a esta transacción suponga que se va a cumplir lo que aquí se dice tengan seguridad que

en esta cámara con más iniciativas al respecto nada más muchas gracias eskerrik asko

en dos mil trece se produjo un debate sobre la cuestión que hoy volvemos a debatir al anunciar e i te be la reducción de diez contratos en radio vitoria medida materializada posteriormente a pesar del mayoritario rechazo de este parlamento y de las instituciones

un recorte de plantilla del veinte veinticinco por ciento

otras emisoras del grupo público en esta nueva iniciativa del grupo socialista se pretende

punto anterior al recorte de dos mil trece digamos que lo demás es publicidad propaganda y campaña electoral el fundamento de la iniciativa es en concreto

que radio vitoria cumple desde hace muchos años una función de servicio público que ahora por una decisión absurda y arbitraria de la dirección de e i te be puede verse

y decíamos que no tiene ningún sentido ni ninguna lógica que de un plumazo

un veinticinco por ciento la plantilla y que tiene mucho menos sentido que esta amenaza de despidos de la nueva directora de e i te be se haga sin presentar ningún estudio

y justifique sus decisiones ningún estudio sobre radio vitoria y mucho menos sobre la globalidad del grupo e i te be qué era lo que le pedíamos

que la nueva dirección de la radio televisión pública nos presente en el plazo de tres meses un estudio de reorganización y redimensionamiento del grupo

que era lo necesario y a día de hoy seguimos pensándolo porque nosotros si creemos que hay que adelgazar

e i te be pero no precisamente en radio vitoria una emisora que sí cumple con lo que nosotros consideramos que debe ser una radio pública de calidad y de servicio público más allá

de por dónde recortar el centenar de cargos nombrados a dedo jefes y jefecillos decíamos que controla a todo el grupo que suponen el diez por ciento de la plantilla actual

cuatro millónes y medio de gasto las delegaciones de pamplona y baiona que nos suponen varios millónes más de gasto para informar de cosas

no le interesan o las cadenas de televisión a través de una reestructuración más que necesaria y decíamos que no se pueden hacer así las cosas y decíamos que antes habrá que hacer un estudio serio y riguroso de todo el grupo de la plantilla de todo el grupo de los gastos de compras de los gastos de programas que nadie ve ni escucha ni interesan de realities que no tienen nada de servicio público de la participaciones en algunas de las empresas más que dudosas sobre dimensionados y muy bien pagados esto era lo que básicamente decíamos hace dos años y hoy seguimos defendiéndoos en relación a la enmienda transaccional

durante el debate estamos básicamente de acuerdo con lo que se propone más allá de que nosotros

queríamos recordar que sigue pendiente la puesta en marcha de esa comisión para analizar e i te be a fondo y tomar las medidas necesarias para volver o tratar de recuperar a una e i te be que pueda ser considerada que efectivamente ejerce un servicio público de calidad aquella iniciativa en la que pedíamos la creación de aquella comisión se aprobó hace algunos meses y todavía no se ha reunido por lo tanto es un asunto que sigue pendiente pero más allá de eso evidentemente compartimos

transaccional en todo caso creo que hay que realizar una visión global de los asuntos pendientes

en nuestra opinión siguen siendo urgentes a día de hoy cada día que pasa son más urgentes hay que tomar una serie de medidas en relación a e i te be

la consejera pues en fin me gustaría explicar cuáles son esas medidas que nosotros consideramos absolutamente

hay que reformar la ley de e i te be hay que cambiar la forma en que es elegido el director general o la directora general de e i te be hay que despolitizar su dirección hay que despolitizar el consejo de administración

hay que redimensionar la estructura del ente hay que racionalizar el ente hay que despolitizarlo a día de hoy es evidente que sigue siendo

al servicio del partido nacionalista vasco y hay que hacer que cumpla los principios que debería cumplir y que sigue sin cumplirse a día de hoy profesionalidad objetividad informativa veracidad

informativa señora consejera ya que está usted aquí presente en este pleno asistiendo atentamente a las cosas que estamos diciendo la politización de e i te be a día de hoy es una desfachatez y una vergüenza a día de hoy e i te be está al servicio del partido nacionalista vasco y esto hay que cambiarlo radicalmente y de manera urgente podemos

algunos de los hechos ocurridos durante las últimas horas incluso durante los últimos días e i te be ha decidido dejar fuera a upyd de los debates de la campaña electoral a pesar de que upyd tiene representación en el parlamento vasco y a pesar de que upyd tiene representación

evidentemente esta decisión vamos a recurrirla a lo largo de esta semana radio euskadi

una ronda de entrevistas con los diferentes partidos políticos vascos izquierda unida partido popular partido socialista de euskadi bildu

y ha decidido dejar fuera otra vez a upyd esto es una desfachatez y una vergüenza y no van a conseguir que nos callemos no van a conseguir

que upyd reduzca sus críticas al partido nacionalista vasco o al gobierno vasco es una desfachatez y una vergüenza que no estamos dispuestos

minuto a minuto sobre el concierto económico qué partidos políticos asistieron a ese debate partido nacionalista vasco bildu partido socialista de euskadi partido popular ciudadanos y podemos

y a quién se decide dejar fuera otra vez a upyd en un debate sobre el concierto económico el único partido político que critica claramente

la dirección general de e i te be decide dejar fuera para que no pueda explicar cuál es su posición en relación a esa cuestión esto es

una vergüenza y llueve sobre mojado seis partidos políticos debatieron ayer sobre el concierto económico y miren ustedes por dónde quién queda fuera upyd el único partido político que dice algo distinto en relación a todos los demás esto es objetividad esto es pluralidad esto

acaba de mandar el programa minuto a minuto sobre la emisión del programa de ayer anoche

una clase magistral sobre el concierto económico esto es objetividad y los partidos políticos que pensamos distinto y resulta que e i te be está haciendo apología de una posición concreta de una persona que fue allí a explicar

cuál es su posición sobre la cuestión esto es una vergüenza esto es una vergüenza señora consejera ya hablaremos por cierto de la nota de prensa que ha emitido hoy la fiscalía en relación a su comparecencia de ayer en la comisión de educación ese es otro tema pero este tema también

de radio vitoria es un asunto importante podemos hablar de las decisiones que tienen que tomarse en relación a esta cuestión pero lo que es inadmisible es que tengamos a una que esté al servicio del partido nacionalista vasco y del gobierno vasco y que trate de vengarse de esa manera hacia upyd

que osa criticar al partido nacionalista y al gobierno vasco una auténtica vergüenza no vamos a tolerarlo nos parece

por desgracia este no es un debate nuevo lo ha definido usted muy bien

toda la cámara o de una gran mayoría de la cámara respecto a un tema que socialmente era sensible el gobierno desoye a la cámara y se tiene que reiterar el debate de dos mil trece a dos mil quince y seguimos en el dos mil quince y hay que volver a traerlo encima de la mesa

no se está escuchando a este parlamento comparto con usted el análisis histórico que ha hecho en gran parte de su iniciativa porque creo que el problema está encima de la mesa pero no puedo compartir las soluciones las soluciones no pasan

en la que ha dejado el gobierno del partido nacionalista vasco a radio vitoria

no había un problema económico no se pusieron encima de la mesa números para decir hay que despedir a gran parte de la plantilla veinte veinticinco por ciento de los profesionales de la casa es más gran parte de esos profesionales han sido sustituidos por otros y ahí viene el problema

y también estoy de acuerdo con usted señor unzalu en su frase etb era una radio hecha por nacionalistas perdón una televisión hecha por nacionalistas para nacionalistas y ese es el problema de radio vitoria

a la radio señora consejera desde niño y recuerdo perfectamente la cercanía de radio vitoria era una emisora muy local muy vitoriánica muy alavésica

las noticias muy cercanas las noticias de tu ayuntamiento las cosas que han ocurrido en la calle los problemas de tráfico los problemas del tiempo

los comentarios de las cosas que ocurren en la ciudad en las familias de la ciudad vitoria es una ciudad moderadamente pequeña y radio vitoria era quien daba ese servicio la única que lo daba y eso ustedes se lo han cargado

me sorprende que hoy se unan a la enmienda transaccional porque en realidad lo que tendrían que hacer era levantarse y aplaudirse a ustedes mismos

han conseguido transformar lo que era radio vitoria cuando la sociedad les estaba pidiendo reiteradamente y por todos los medios y por todos los altavoces posibles que no se trasformara radio vitoria en algo más

no voy a entrar en el tema de la independencia política de los profesionales porque merecen mi respeto pero sí le voy a contar mi situación personal no es una cosa que haya oído a mí cuando he llegado a entrevistas a radio vitoria me han dicho que no me lo tome a mal que eso más que una entrevista es un debate

esa es la realidad quieren convertirlo en un instrumento de adoctrinamiento no en una radio cercana determinadas opciones políticas no tienen el apoyo que debieran tener o al menos la imparcialidad de los profesionales vamos a volver a dotar a la plantilla de e i te be perdón de radio vitoria de los medios humanos que tenían sí

a los profesionales independientes que es de lo que se trataba

más gasto luego el problema no era económico vuelvo a reiterarlo

esa radio a la medida de unos intereses de gobierno no a la medida de la necesidad de la ciudadanía y por desgracia a mis argumentos les darán la razón los índices de audiencia próximos cuando se publiquen

nos levantamos a las mañanas los vitorianos nos podíamos levantar y quienes llegan a vitoria a primera hora de la mañana

líder de audiencia indiscutible había que evitar esos contratos para un programa que se hace en castellano es fundamental

sean bilingües un programa que se hace en castellano es

se contratan programas a otros profesionales si por alguna razón de la relación de puestos de trabajo había que sustituir a esos profesionales por alguien que tuviera

se puede hacer pero se pueden mantener los programas no es que el interés no es la plantilla el interés es eliminar ese tipo de programación veremos

profesional con todos mis respetos que lleva esa franja horaria ahora

eso es una pérdida para la sociedad porque era un programa amable sin tintes políticos era un programa divertido para levantarte a las mañanas con una sonrisa

por eso pienso yo que restituir el número de trabajadores no es la solución cuando hay profesionales que llevan años y años haciendo radio

y se les sustituye por personas que son bilingües que lo importante es que sean bilingües da igual que hayan trabajado en radio o no volvemos a lo de siempre

luego que me hable como pueda pero lo importante es que tenga conocimientos de medicina no sustituimos a periodistas con una dilatadísima experiencia de trabajo líderes de audiencia por personas que efectivamente y a todos nos parece bien que nuestros funcionarios

no es que eso es secundario eso a la hora de hacer los exámenes no era lo importante

de la calidad de los programas que se ofrecen y cada vez y eso no me lo podrán negar hay mayores desconexiones de esa radio local a la programación de radio euskadi que yo no digo que sea malo

por qué ese afán en no mantener la programación propia si yo mañana me voy a vivir a durango

me voy a vivir allí y me pongo a trabajar en una emisora local y quiero hacer programas de sociedad de durango duraré dos telediarios

yo no conozco durango y me va a costar un esfuerzo ímprobo volver a situarme en esa

por qué había que despedir a estos profesionales para generar menos producción propia que ese era el motivo de la enmienda a la totalidad que habíamos presentado nosotros

haciendo desconexiones con la radio de todas y todos los vascos

pero para eso ya tenemos la opción de seguirla en los diales desde los que se oye aquí

y lo importante que ha dicho siempre este parlamento es que hay que mantener una radio cercana que era una radio local que no es una radio autonómica ni es regional es una radio local dinero hay medios hay por qué se ha hecho no lo sé van a escuchar

no se siga repitiendo yo ya no le pido que se vuelva a contratar a toda esa gente que se ha despedido y que se vuelva a la programación anterior que desde luego tendría

pero sí le puedo pedir que de ahora en adelante aquellos trabajadores que hacen la radio en directo no los que están

terminando su vida laboral y se vayan jubilando desde luego que no sean sustituidos por una desconexión con radio euskadi es que no tiene ningún sentido eso no es radio vitoria
y eso no es desde luego lo que en reiteradas ocasiones les ha pedido este parlamento gracias eskerrik asko ruiz de arbulo jauna

diez minutos seguidos hablando de e i te be sin pedir la dimisión de su directora está usted bien luego en el siguiente turno continúo entonces porque suelo acostumbrar a pedir cuatro o cinco veces en cada intervención que tiene

baztertuta egon hemos firmado con socialistas y con bildu una enmienda de transacción pero creo que estamos de acuerdo en los tres puntos de la enmienda pero señor unzalu no estamos de acuerdo ni en la historia

esos puntos ni tampoco en el título de la propuesta ya le dijimos que desmantelamiento y creo que ustedes lo saben que así se titula su propuesta desmantelamiento de radio vitoria es un substantivo muy catastrófico muy destructor para nada indica que lo pasa en radio vitoria radio vitoria no se ha desmantelado

y radio vitoria tampoco se va a desmantelar radio vitoria continúa todos los días

continúa apareciendo en primer o segundo lugar en casi todos los estudios de audiencia dependiendo de si es el o si es el cies todos sabemos que ha habido una reducción de plantilla en radio vitoria

usted decía que el veinte por ciento mis notas son que es el quince por ciento en los últimos años pero tenemos unas causas que son las mismas causas que provocaron el ere de eusko

dice lo siguiente la que ampara aquel ere que es lo más parecido a la suspensión

se concluye de que sí concurren causa económica bastante para justificar el despido colectivo eusko irratia y radio vitoria se encuentran

y previsión del quince se encuentran asimismo en situación de pérdida situándose en causa de disolución

a pesar de las medidas que se han adoptado para reducir los gastos las mismas son insuficientes en definitiva

proporcional y adecuada para cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria

historia de radio vitoria todos sabemos que al principio de radio euskadi y radio vitoria

un conductor de dicho coche un técnico de la emisora y un redactor a los quince veinte años

con su teléfono móvil podía hacer la función que hacía antes el técnico el redactor y también el chofer con el coche también se mantiene la teoría de que para mantener

un locutor que mantenía la locución y que mantenía la emisión y un redactor que leía las noticias

es el redactor que lee noticias es el locutor que mantiene la comunicación con los oyentes

puede también hacer los servicios que antes hacía el control de radio nosotros estamos en contra del capitalismo salvaje de las radios privadas que evidentemente a medida que se inventaban aparatos nuevos iban

en sus emisoras ese es un extremo es decir creemos que no se debe aprovechar tanto la tecnología para reducir la plantilla

de acuerdo con las peticiones de la programación y de la tecnología tampoco nos parece bien qué haríamos si por ejemplo en la radio pública

por mor de los avances tecnológicos readaptarlos en primer lugar

la radio pública aunque su objetivo evidentemente no es la rentabilidad como las privadas sino que su objetivo es un servicio público también tiene que tener cierta

sobre todo a los nuevos tiempos de la tecnología de la comunicación

el señor arbulo decía en su enmienda que había que priorizar los contenidos locales sobre la programación regional con el objetivo de evitar la pérdida de audiencia

porque evidentemente los oyentes de vitoria no son unos marcianitos que solo quieren saber de vitoria quieren saber lo que pasa en bilbao en donosti

deme usted veinticuatro horas de contenido de vitoria porque ni la ciudad genera tanto contenido ni tampoco le interesa al ciudadano que van por ahí los tiros pero de todas formas le voy a dar unos datos para que vea que su petición

no tiene pies ni cabeza cuánto cree usted que dedican al tema alavés y vitoriano las radios privadas pues se lo digo yo tres horas al día una octava parte del día que es algo así como un doce por ciento

dedica aproximadamente quince páginas sobre cada noventa y seis páginas de la edición diaria que es también un quince por ciento radio vitoria dedica dieciséis horas al día que son dos tercios que son sesenta y seis por ciento fíjese en la comparación cualquier radio privada que opere en vitoria o en bilbao o en donostia

el periódico de mayor tirada un quince por ciento radio vitoria sesenta y seis por ciento y ustedes todavía piden más contenido local

más caro de la radio con lo cual encareceríamos el coste de la radio

y que evidentemente se gasta bastante más de lo debido yo creo que la programación local de radio vitoria está perfectamente bien

medianamente bien proporcionada el número de trabajadores con el número de tiempo local

calificar de rancio el provincianismo porque se puede

vitorianismo frente al imperialismo informativo guipuzcoano y vizcaíno

deberíamos de estar en álava agradecidos de que el ente público cuando compra la emisora radio vitoria a la caja de ahorros municipal lo que hace es en lugar de decir lo que hubiera hecho cualquier empresa privada yo

me aprovecho de sus frecuencias y de sus antenas y a través de las antenas esas

de que radio vitoria es un elemento diferencial en euskadi que

no nos importa mucho y sin embargo no tenemos ninguna radio local pública en gipuzkoa ni tampoco tenemos ninguna radio local pública

a que en lugar de quejarse siempre de ese constante agravio comparativo se den cuenta de que tienen un premio

pública local que pagamos todos los vascos y que escuchan solo los vitorianos por motivos geográficos y por motivos

entonces están siempre quejándose su diputado general decía hace un año

al mes siguiente decían que radio euskadi había hablado dos minutos más de

que del deportivo alavés dejemos a los jefes de información de deporte de radio euskadi radio de vitoria que decidan ellos mismos

en su tarea sobre todo lo que le acabo de decir el sesenta y seis por ciento del tiempo de radio local con ese tiempo da para aburrir a los oyentes no hace falta más tiempo para radio vitoria vitoria no genera tanta información como para estar

hay un sesenta y seis por ciento lo cual equivale a un coste muy fuerte y lo que le he dicho antes radio vitoria como un motivo para protestar contra e i te be digamos a los alaveses que radio vitoria es un regalo que e i te be nos da

en nuestra ventaja respecto a vizcaínos y respecto a guipuzcoanos besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

señor ramírez escudero cada vez que usted habla de radio vitoria es que se consagra

ha ido a su escaño diciendo que radio vitoria es un regalo como si los

para que esto lo tengamos no no eso ha dicho usted según iba acabando

por el principio de su intervención que realmente creo que su firma de la enmienda transaccional responde a lo que yo pensaba lo que pasa es que no es nuestra actitud el negar a nadie que dice que está de acuerdo

pero usted ha dicho de que no van a corregir el rumbo de que todo está muy bien usted ha dicho de que van a seguir en la misma cuando precisamente en esta enmienda transaccional que usted ha firmado lo que se dice es lo contrario es que se corrija el rumbo

vaya en la deriva que hace dos años se le está llevando eso es lo que se dice y usted dice que no que va todo muy bien

es un gesto electoral es decir para no crearse más tensiones en la sociedad alavesa y como estamos

a menos de un mes de las elecciones generales usted ha firmado hoy para lavarse la cara pero que en definitiva

lo mismo que usted nos dijo aquí el seis de junio de dos mil trece un día que por cierto tampoco fue glorioso usted hizo aquí una serie de desconsideraciones sobre la plantilla

la respuesta contundente de los propios trabajadores de radio vitoria

usted aquel día dijo aquí en este estrado que la dirección de e i te be mantendrá la programación local actual de radio vitoria y la plantilla que tiene en la actualidad

continuando en su intervención dijo repito el compromiso de que va a seguir existiendo la marca radio vitoria con su programación habitual

pues lo digo yo pero lo dicen también los propios trabajadores de radio vitoria veintitrés profesionales con una larga trayectoria con una larga experiencia y precisamente estos trabajadores el día veintinueve de septiembre

que los contenidos que se dan en radio vitoria

para realizar ciertas labores porque se les están dejando con menos medios todo eso lo dicen ellos yo lo creo estoy de acuerdo pero es que ellos que están allí en la propia radio lo dijeron el veinticinco de septiembre creo señor ramírez escudero que usted

mucho me temo que vamos a seguir hablando de radio vitoria porque

no va a haber corrección y yo pensaba la verdad que cuando esta mañana hemos firmado pensaba que la intención de usted de su grupo

era enderezar lo que se está llevando por mal camino en radio vitoria pero bueno como digo a los hechos yo he dicho en mi primera intervención espero que su firma asegure que se va a cumplir con esto vamos a ver espero que su intención que su forma

del ente radio televisión y al señor arbulo la verdad decirle que entre lo que usted ha dicho y lo que nosotros aparte de algunas consideraciones sobre la radio vitoria que usted ha llevado un poco

eso tampoco es más importante pero es que sinceramente yo creo que no hay tanta diferencia

entre lo que nosotros planteamos es más yo creo que es lo mismo y que si usted desde el martes que le pasé nuestra propuesta de enmienda transaccional hubiera hecho aportaciones seguro que hoy estábamos votando

para conseguir que radio vitoria no se desmantele para conseguir que radio vitoria se mantenga en ese carácter público local y generalista que por lo que usted ha dicho podemos compartir porque mire usted usted dice en su enmienda de totalidad reclama medios efectivos que garanticen la continuidad de un servicio público y en la enmienda que nosotros hemos aprobado que hemos firmado y que vamos a votar a continuación décimos

a un carácter de radio generalista y local referente para la sociedad alavesa no sé semánticamente por supuesto que no décimos lo mismo pero en la idea yo creo que estamos absolutamente de acuerdo

que garanticen la continuidad del servicio público de calidad y nosotros décimos que radio vitoria debe contar con una plantilla que precisamente asegure eso efectivamente hablamos de plantilla pero

porque queramos o no mantener una serie de puestos de trabajo

que la plantillan entre otras cosas asegura que el servicio de calidad se pueda mantener por lo tanto le invito señor ruiz de arbulo a que se sume a la mayoría prácticamente más que mayoría absoluta de esta cámara y que voten la enmienda de transacción porque creo que sinceramente no hay diferencia en el planteamiento en la idea

gracias presidenta señor unzalu agradezco su mano tendida pero

no puedo agarrarla no puedo agarrarla porque usted mismo ha empezado su intervención diciendo que no se cree

enmienda transaccional y yo tampoco y yo tampoco yo no me creo por mucho que ponga en el texto que hay grupos que los firman y que han venido aquí ha decirnos que radio vitoria es un regalo de los vascos para estos ciudadanos me parece vergonzoso de

me parece tremenda unida a otras que ya había leído de debates anteriores

es curioso que los avances técnicos han provocado que haya despidos en las radios en las radios públicas y en las radios privadas pero parece ser que es una desgracia que avances técnicos solamente haya habido en radio vitoria

esos despidos es decir los avances técnicos los pagan los trabajadores de radio vitoria para mantener a otros del ente o sea que

que justifica un ere porque efectivamente con los ingresos del ente no se cubren los gastos se atrevería usted a pasar por ese tamiz a todo el grupo

a las empresas públicas dependientes del gobierno vasco y de otras instituciones del gobierno del estado de cualquier comunidad autónoma de los ayuntamientos se atrevería usted

la resolución judicial aceptará los despidos pero usted tiene el valor de decir que eso solamente debe ocurrir

un regalo de quién no pagamos impuestos aquí o qué no tenemos derecho a mantener esa emisora no se compró con ese fin de mantener

de la producción se dedica a temas locales suficiente suficiente a criterios de quién al suyo no al de este parlamento

que no lo son yo le pido producción propia evidentemente tendrán que conectar con otros servicios porque hay muchísimas noticias que hay que dar cobertura

de otras partes del territorio claro que sí pero ya lo que más me ha dolido es que justifique y ponga en el mismo plano

que el de un señor que presenta un programa de máxima audiencia con todos mis respetos hacía el chofer ahora no es necesario pero usted dice que es un avance técnico y que a ese señor hay que despedirle y que esas cosas pasan

solo en radio vitoria no en el resto del grupo y ese profesional lo despedimos por qué por un avance técnico qué avance técnico si es líder de audiencia antes deberían haber caído otros

o igual es que eran excesivamente independientes y a usted eso no le gusta gracias eskerrik asko ruiz de arbulo jauna

señor unzalu no hemos venido ni a mentir ni a hacer una firma porque estamos en tiempo preelectoral

nosotros no queremos mandar en e i te be nosotros no queremos decir cuál es la plantilla de radio vitoria

el señor arbulo cuál tiene que ser la programación local nosotros lo que décimos es que tienen que ser los sindicatos y la dirección de e i te be quienes pacten esto y le leo que ya se lo sabe usted el tercer punto de nuestra enmienda

las medidas que permitan el desempeño de la actividad de radio vitoria en condiciones optimas de calidad teniendo en cuenta el carácter público de la emisora

quiere ser el que diga cuál es el tope de plantilla de radio vitoria

a los profesionales de la radio quiénes tienen que hablar a qué hora tienen que hablar

señor arbulo no me entienda mal lo del regalo yo lo que he dicho es que radio vitoria emisora pública local

la única emisora local publica que hay en euskadi

entender el hecho de que radio vitoria exista como algo bueno del ente público para álava no como algo malo que se está siempre reclamando más tiempo local y que se está siempre utilizando como ariete de lucha contra todo lo que signifique

e i te be yo creo que la programación actual de radio vitoria es una programación buena en cuanto a contenido en cuanto a cantidad de temas locales

por pedir porque ya le he dicho antes todas las emisoras europeas en los últimos cuarenta año han ido al revés han ido solicitando

también le gusta aparte del tema local enterarse de todos los demás no vamos a llenarle los oídos simplemente de temas típicamente alaveses habrá que decirle que el mundo existe a su alrededor y

está completamente servido entonces yo creo que no hay que decirles

que se junten que hablen y que ellos delimiten cuál es la plantilla ideal de radio vitoria y cuál es programación local de radio vitoria señor arbulo no se queje de que solo ha habido

proporcionalmente más o menos la ausencia de contrataciones podrá ser un punto más un punto menos pero no solo ha sido

otra vez más a radio vitoria no no porque también hubo un ere que no le afectó a radio vitoria en radio vitoria hubo otro tipo de contratos cancelados

con lo cual no nos han castigado los directivos de radio euskadi

bien ayer mismo tuvo lugar el día internacional contra la violencia de género y la verdad es que a lo largo del año hay ya pocos días en los que no se

y se celebre alguna causa social pero pocas concitaran tanta unidad y tanta atención como

violencia de género creo que es un éxito colectivo y creo también que sino hubiera tantas políticas

muchas administraciones desde hace tanto tiempo no se conseguiría concitar tanto interés y tanta atención de hecho en cuanto finalice este punto del orden del día y este pleno va tener lugar la lectura de una declaración institucional entonces con este ambiente de fondo traigo a la consideración de este pleno una iniciativa que

mejorar en alguna medida alguna política concreta hoy por suerte este cada vez más

de todos no caer en la tentación de hacer de la lucha contra la violencia de género un tema ideológico

desde ninguna idea concreta y eso se traslada también a la opinión pública de hecho hemos conocido estos días una encuesta

de vascos que consideran inaceptable la violencia de género creo que con estas cifras tenemos que estar orgullosos

contra esta lacra en cualquier caso quienes gobiernan tienen que llevar a cabo

actuaciones destinar recursos económicos recursos humanos y también evaluar

corregirlas o mejorarlas en función de los resultados de esas evaluaciones y esta iniciativa va precisamente de eso esta iniciativa lo que pretende es evaluar y emplazar al gobierno a que evalúe antes de que finalice

legislatura un programa que es muy reciente de este verano que se ha puesto en marcha dentro del marco del programa

las diputaciones también los ayuntamientos a través de eudel y también e i te be y

y pretende evitar las agresiones sexistas en un colectivo muy concreto que es el de los jóvenes y también

fiestas ocio y diversión hemos asistido con preocupación todos los grupos políticos a estudios y datos que

décadas hubiéramos creído impensable y es que iba a seguir perviviendo la desigualdad entre los jóvenes cuando creíamos que esto era algo que lo arreglaría

es más también sigue habiendo prejuicios latentes entre los jóvenes que hacen que se pueda crear un clima favorable a las agresiones sexistas y a la violencia y por eso era necesario y obligaba al gobierno vasco a tomar medidas

para con estos colectivos y precisamente este programa al que se refiere

surge precisamente de esa necesidad de implicar a la juventud contra la violencia machista y hacerlo en aquellos contextos en los que

u otros motivos se dan unas condiciones más favorables y más vulnerables a que se cometan este tipo de agresiones por tanto se trata de promover actitudes y comportamientos basados en el respeto en la igualdad y en la autonomía a través de esta iniciativa que se puso en marcha en verano lo que se diseñaron y se distribuyeron folletos entre

las agresiones pegatinas carteles también se hicieron recomendaciones sobre qué música escuchar o cuñas para poner en espacios

talleres es decir que se tuvieron en cuenta muchas medidas y muchas iniciativas

recomendaciones de música quizá fueron las que tuvieron más proyección mediática por originales en alguna medida pero también porque suscitaron

a dar una lista de canciones para poder pinchar en establecimientos hosteleros y en recintos

y esto pues no gustó a muchos bares hasta tal punto que obligó al gobierno vasco a tener que salir a aclarar

medida que no era una cuestión de gustos musicales ni siquiera era una medida intervencionista sino que era una cuestión de mensajes y de recomendaciones

tuvimos que volver a condenar y a denunciar agresiones en fiestas que además tuvieron mucha repercusión tanto en las tres capitales vascas como en numerosos municipios del país vasco como

y esto desde el grupo popular nos dio qué pensar porque a pesar de

que los objetivos que se perseguían pues no se conseguían o al menos tenían margen

en cuenta que pues el contexto en el que se debate esta iniciativa con el día de ayer tan

era lógico que llegáramos también a un acuerdo bastante compartido y saldrá adelante una enmienda transaccional que lo que hace es

acabe la legislatura evalúe y analice el programa al que nos referimos dirigido a gente joven en contextos festivos y de ocio y que pueda sumar y reforzar más compromiso de más instituciones y de más ayuntamientos para que se traslade un mensaje claro y unificado

mejor y cuando las proponemos lo hacemos con el ánimo más constructivo que somos capaces sabemos que por el tema que es si quisiéramos podríamos

o no e incluso mientras preparaba esta iniciativa hemos descubierto alguna otra cosa que confío que se

rápido pero en aras a no

con el estado de ánimo que nos embarga estos días con esta causa compartida

nos felicitamos es porque vaya a salir adelante esta iniciativa con esta enmienda transaccional

encuesta del gobierno vasco también traslada otras conclusiones que han alarmado o que han preocupado al gobierno vasco y a la gente en general una de ellas la de que

consideran que se dan denuncias falsas en torno a la violencia de género cuando sabemos que esto no es así

sino que las cosas a veces se perciben de manera distinta a como son y es ahí donde creo que las políticas públicas en materia de violencia de género

intervenir este estudio como tantos otros de los que dispone emakunde y dispone el gobierno vasco da muchísima información sobre

medidas nuevas desde luego esta que acabo de decir de las denuncias está claro que debiera ser inspiradora de nuevas medidas

me resulta preocupante que más de la mitad de los vascos por ejemplo no hayan oído hablar

también creo que habrá que hacer algo al respecto pero relacionado con el tema de esta iniciativa el de la gente joven y en contexto festivos y de ocio

que el abuso del alcohol y las drogas están detrás de la mayoría de los actos de violencia machista contra las mujeres este consumo y abuso

en contextos festivos puede servir de coartada por desgracia a quienes no respetan las libertades fundamentales de las mujeres y atentan contra ellas con actitudes y agresiones sexistas por tanto mientras haya margen mejorar estas iniciativas y estas políticas y mientras los estudios nos sigan desvelando que tenemos cosas que mejorar creo que no debemos cejar en el empeño y esta iniciativa que presenta el grupo popular

gracias presidenta bueno en este tema en lo que tiene que ver con la violencia de género en la

hagan todo lo que pueden para erradicar este grave problema y este terrorismo que existe también en nuestro país y que atenta fundamentalmente contra las mujeres creo que aunque en el contenido de la iniciativa original y en lo que es en el tema en general probablemente estemos todos de acuerdo y creo que estamos todos de acuerdo y de ahí viene el amplio consenso que

este tema como otros creo que debiera ser uno de esos temas a los que nunca se les aplicará recortes económicos creo que se ha sufrido unos recortes económicos

en temas de políticas de sensibilización en programas concretos y creo que aunque reconozco que la parlamentaria ruiz ha traído una iniciativa aparte de oportuna necesaria justificada y con todos los parabienes que haya que decir también es justo reconocer que el punto de partida

porque esta es una de las políticas que mayores recortes económicos ha sufrido en los presupuestos generales del estado partiendo

muchas veces denostada a la que se le ha criticado por activa y por pasiva el que es el causante de todos los males de españa

eslabón al que todos acudís como parlamentarios

creo que fue la persona responsable de la primera ley que se llama

de medidas de protección integral contra la violencia de género creo que dio el cambio cualitativo más importante dentro de las políticas que luchan contra la violencia de género y creo que al cesar lo que es del cesar y al señor zapatero se le puede hacer responsable de muchas cosas pero creo que también

ante algo como esto porque además puso la política relacionada con la violencia de género como la política prioritaria dentro de las políticas de igualdad

de los partidos sino el partido que puso en la agenda política como primera prioridad el tema de la violencia de género por lo tanto nunca un socialista hubiera hecho los recortes económicos

dicho esto por tanto como he dicho compartimos el contenido de la iniciativa aplaudimos el acuerdo alcanzado es verdad que el gobierno vasco ha puesto en marcha un programa

se firma en julio por lo tanto es justo darle un tiempo de margen para poder evaluar lo que se programa del gobierno vasco es capaz de recabar y ver cuáles son

quizás que aplicar otras nuevas herramientas para que eso funcione mejor y efectivamente

pues dice cosas muy preocupantes es verdad que al mismo tiempo es contradictorio porque al mismo tiempo que más de un noventa por ciento reconoce la violencia de género como un problema también hay un cuarenta por ciento que duda de que las denuncias sean ciertas

se pone en cuestión esas denuncias que vienen por parte de las mujeres es verdad que parecía que en este tema estaba todo hecho parecía que se habían reconocido

pero efectivamente queda mucho por hacer comparto y compartimos la parte de la que emakunde ha hablaba que es fundamental la pedagogía

esa asignatura de educación para la ciudadanía en la que los valores de la sociedad

donde desarrollan las educaciones de nuestros jóvenes porque es verdad y el muy preocupante como decía la señora ruiz que nuestros jóvenes consideren que criticar la vestimenta o pretender decidir sobre la vestimenta de su pareja es normal como

propios móviles no forma parte de la violencia de género y todo esto forma parte de una situación preocupante a que desde luego la administración tiene que intentar dar solución

la transacción a la que hemos llegado recoge la preocupación que tiene este parlamento reconoce que las herramientas que ha puesto el gobierno vasco para intentar luchar contra esta lacra reconociendo que hay que dejar que funcionen y cuáles

pero también creo que la labor que se tiene que hacer desde las propias casas desde los propios colegios y también desde la administración será un punto fundamental

cosas que lo consideran normal y que desde luego está muy lejos de la igualdad entre hombres y mujeres por lo tanto pues celebrar el acuerdo alcanzado

que se está poniendo las herramientas para que esto ocurra y luego en esto como en otras cosas que esta política de igualdad y de lucha contra

de los que nos acordamos o de las que la ciudadanía hace eco cuando tenemos sobre la mesa noticias como las que tenemos últimamente demasiado a menudo

de la agenda política de todos los gobiernos de los ayuntamientos hasta el gobierno central entre medio todas las administraciones

gobierno que entienda que debe representar a sus ciudadanos nada más muchas gracias eskerrik asko rojo andrea

el contenido de la transaccional comparto todo lo que prácticamente se ha dicho por parte de las intervinientes y seguramente también

los que intervinientes que vengan a continuación hay que hacer todo lo posible para acabar con la lacra

y la violencia machista es uno de los problemas fundamentales que tiene este país por lo tanto hay que caminar juntos y entender que este es un problema de primera magnitud

poner en marcha todas las herramientas que sean precisas para acabar como digo con esta lacra que nos avergüenza a todas las personas de bien seamos

horretan quienes con sus recortes y reformas se han cargado las políticas de igualdad en el estado español políticas clave para la erradicación de violencias machistas quienes han fomentado la vuelta acelerada de las mujeres al hogar

no están bajo nuestro punto de vista en posición de plantear este tipo de cuestiones

una enmienda que para nosotras sitúa la erradicación de todo tipo de violencia machista

orden situarlo en la agenda política ampliar la mirada y no los contextos

demás grupos nos hablan precisamente de eso de continuidad la continuidad que hace que este tipo de respuestas machistas no se aborden de manera integral no se le da la respuesta que tenemos que darle saben que es lo que necesitamos

en dos cuestiones por una parte responder a las situaciones de emergencia que se dan para frenar la precarización de la vida de las mujeres medidas socioeconómicas claras firmes y feministas y por otra parte las que prioricen la vida y los cuidados frente al enriquecimiento económico estamos viendo

de la violencia machista y a pesar de tener aspectos positivos hay que destacar que se despolitiza el problema negando el conflicto real y las relaciones de poder que las sostienen

en términos de poder en las políticas actuales de atención a la violencia tenemos que empezar a hablar de derechos humanos en la violencia machista porque solo desde el enfoque de derechos humanos se coloca a las mujeres como titulares de derecho y por tanto sitúa a las instituciones como garante de esos derechos con todos los medios a su alcance

de género que denominan oficialmente a nivel estatal nos afecta también en esta comunidad autónoma

enfoque empoderador sino más bien a un enfoque asistencialista en las que las mujeres son vistas como beneficiarias que tiene que encajar en ese cliché el enfoque de derechos humanos precisamente permite precisamente salir de este enfoque asistencialista de hablar de las mujeres como usuarias de recursos de violencia y considerar la violencia no como un problema social sino como una cuestión de derechos políticos civiles culturales y también sociales también hay que tener en cuenta las múltiples discriminaciones como pueden ser mujeres migrantes en situación administrativa irregular mujeres con diversidad funcional incluso mujeres con perfiles socioeconómicos altos a los que no están siendo atendidas porque sus recursos no encajan en las prestaciones de servicios sociales voy a poner algunos ejemplos para que veamos las grandes deficiencias que existen ahora mismo

denuncia por violencia machista existe la falsa creencia de que los juzgados especializados de violencia contra las mujeres son juzgados especializados en realidad no son especializados puesto que el personal implicado abogadas abogados jefatura fiscalía

no se está haciendo un seguimiento oficial de qué está pasando en estos juzgados no se está rindiendo cuentas de cómo se está funcionando y en realidad los datos que tenemos son

han aumentado en un ciento cincuenta y ocho por ciento las absoluciones y las causas archivadas

en este tipo de parámetros han aumentado los sobreseimientos nada más en getxo el cincuenta por ciento de los casos son sobreseídos y en barakaldo la cifra prácticamente es parecida y aunque la legislación contempla la posibilidad de penar el maltrato habitual perdón es que no oigo el caso de la ley integral

la violencia habitual y esto lleva a que muchas mujeres tengan un gran suplicio a la hora de denunciar los procesos judiciales el sistema judicial y en concreto los juzgados

porque resulta imprescindible que sepan las mujeres a lo que se enfrentan cuando llegan a estos lugares necesitan un asesoramiento pre procesal que actualmente no se les está dando la denuncia no puede entenderse como un fin sino como un medio por no hablar

infraestructuras con las que nos encontramos a día de hoy incluso la consejera de seguridad lo admitía las comisarías de la ertzaintza por ejemplo a día de hoy cuando las mujeres presentan denuncias por violencia machista se tienen que encontrar con el agresor

un espacio físico que les diferencie lo mismo también pasa con los juzgados yo misma he acompañado casos de violencia machista de personas cercanas y es

bilbao por ejemplo en el que en una sala de diez metros cuadrados se juntan todas las víctimas de violencia machista con sus abogadas y con sus personas allegadas para en el poco tiempo que tienen estudiar los casos

pero de manera obligatoria porque no tienen ningún tipo de intimidad recordemos además que la ley estatal solo contempla ojo la violencia ejercida por la pareja o la expareja

en este caso se han duplicado porque hablamos oficialmente de cuarenta y ocho mujeres asesinadas en el estado español según esta ley pero hay noventa y tres feminicidios este año dada la enmienda presentada por el resto de formaciones que por cierto ni por deferencia han hecho llegar la enmienda a eh bildu pero bueno me parece lógico porque partimosde planteamientos diferentes hay que insistir en esa necesidad

pasos firmes de dar una respuesta integral de hacer una estrategia integral no parchear porque no se trata de un contexto no se trata de un contexto

seguiremos parcheando y parcheando perono llegaremos no tendremos voluntad política de llegar a la raíz del problema hacen falta apuestas firmes honestas decididas y por ello euskal herria bildu humildemente propone esta ponencia porque consideramos que es la manera de poner de situar la erradicación de las violencias machistas como un problema político de primer orden y por un aspecto clave que consideramos fundamental a día de hoy por increíble que parezca no existe una interlocución no existe un espacio de discusión colectiva entre las instituciones y el movimiento feminista

que permitan ir tejiendo discursos coherentes que aterricen en ese modelo de prevención y atención integral compartido cada uno con su papel redefinido

como parte de los agentes que trabajan sin descanso por construir vidas libres de violencia machista eskerrik asko eskerrik asko urrea andrea

nace de la urgente necesidad de implicar a la juventud contra la violencia machista promoviendo actitudes y comportamientos basados en el respeto la igualdad y la autonomía se presentó como un espacio seguro libre de agresiones donde impulsar la actitud beldur barik generando respuestas individuales

visibilizando la violencia sexual en las fiestas y reivindicando

un programa donde los chicos tienen un papel muy importante que cumplir para acabar con las agresiones machistas exigiéndoles que deben establecer relaciones de igualdad y respeto con mujeres y hombres

de sus compañeros y que rompan su silencio también cuando increpan se ríen o ignoran comentarios y bromas machistas lesbófobos

como vemos va mucho más allá de decir qué tipo de música tienen que escuchar

beraz modu integral batean abordatzen ari da giza gaitz hau como ya ha comentado la señora ruiz beldur barik es un programa impulsado por emakunde y cuenta con el apoyo y la financiación de las diputaciones forales de araba bizkaia y gipuzkoa y de eudel además cuenta con la colaboración del departamento de educación política lingüística y cultura del gobierno vasco

aborda esta problemática de un modo integral urrea andreari bai gustatuko litzaidake gauza bat

jakitea para terminar desde que se presentó el proyecto beldur barik gunea más de

implementando políticas que buscan implicar a la juventud contra la violencia machista promoviendo actitudes y comportamientos basados en el respeto

responsables de llevar a cabo esas acciones colaborando el propio ayuntamiento con comisiones de fiestas o diferentes movimientos asociativos de un modo abierto

quería comentar algunas de las afirmaciones que han hecho el resto de portavoces decirle a la señora

la ley que llevo a cabo el gobierno zapatero pero ya por contarlo todo también hay que decir que está siendo en esta legislatura cuando se están haciendo

en la que se ha hecho un montón de consideraciones y recomendaciones por parte de todos los grupos para ver cómo mejorar su funcionamiento y quién sabe si

de esta ley y eso no tiene nada de malo simplemente las cosas hay que revisarlas y si se pueden mejorar mejorarse no decía también que el estudio del gobierno vasco era contradictorio no los que somos contradictorios somos

a veces lo que pone de manifiesto es que en ocasiones declaramos cosas que luego a lo mejor

el mundo diría que no luego habría ya y bueno para eso están los estudios sociológicos para ahondar e indagar realmente qué comportamientos qué actitudes y qué valores de fondo existen no también hablaba de la importancia

yo creo que es muy difícil que sea una prioridad no y en parte creo que hasta es bueno que las encuestas

el terrorismo tampoco sea una de las tres principales preocupaciones de los vascos ahora bien cuando preguntas a esos mismos vascos

hoy por hoy esa importancia es muy alta y además ha crecido en los últimos

años a la señora urrea decirle que la enmienda que usted me planteaba a la proposición era crear una ponencia y con eso estamos

en contra porque además hacía un planteamiento general de todo lo que son

políticas contra la violencia de género de hecho en su intervención ha hablado de muchos temas que

y con creces el tema concreto al que se refiere nuestra iniciativa de hecho puestos a hablar de los temas que usted ha mencionado

concretamente ha hablado de temas de justicia y yo la semana pasada en el debate del ararteko hablaba precisamente de cómo llamaba la atención en su informe anual sobre

hijos de víctimas del terrorismo lo que ocurre es que desde luego no veíamos que la fórmula de la ponencia fuera

más trabajo con lo que queda de legislatura y a la señora

ah y otro tema hablaba también de temas ideológicos de la igualdad

pero por eso no desautorizo ni patrimonializo ideológicamente una causa

de género en este caso y a la señora arrizabalaga decirle que he puesto el ejemplo de la música porque fue el que probablemente mucha gente no tendría ni idea de esta campaña porque no iba dirigida a ellos iba dirigida a la gente joven que es

quien se tiene que enterar de este programa pero sí que fue noticia el hecho de la controversia

en fiestas no y por eso lo he puesto porque sí que es verdad que se trabaja muy bien en otras cosas pues con concursos digitales al final con el lenguaje de ellos con las redes

me la había ahorrado en la primera intervención pero ahora ya se la digo no estaría de más

de este programa concreto y este marco estuviera en castellano y en euskera y ahora mismo solo está en euskera con una explicación bastante peregrina para mi gusto que como va dirigida a la gente joven y se supone que todo el mundo es euskaldun

yo creo que hay obligación legal de que esté en los dos idiomas y esa es

que ya de entrada se podía hacer sin mucha evaluación que requiera esa
iniciativa y bueno en definitiva gracias por la enmienda transaccional eskerrik asko ruiz anderea

sí presidenta desde el escaño si me lo permite únicamente para

generales para tratar el tema de la violencia contra las mujeres pero es verdad que en forma de resoluciones políticas no se convierten ni las políticas de acompañamiento ni la atención que reciben de forma psicológica y los lugares donde deben ir las mujeres cuando se sienten amenazadas

pero lo que usted no me puede negar es que los recortes económicos a los que se ha visto sometida estas políticas es una realidad creo que en esta legislatura el gobierno de españa ha hecho un retroceso enorme en políticas

la violencia contra las mujeres y por tanto creo que negarlo es tanto como faltar a la verdad luego únicamente decir a la señora urrea que la negativa a votar

en el caso del grupo socialista no es que estemos en contra de que esa ponencia exista de hecho en la octavo legislatura en este parlamento se desarrolla una ponencia que nació en

y finalizó su informe con la aprobación en pleno en casi dos años y medio después entendemos que es un tema lo suficientemente importante como para que esa ponencia creada pueda llegar a término podamos debatir reflexionar y hacer lo que se tenga que hacer por parte de este parlamento vasco en lo que tiene que ver

y creemos que crearla ahora casi a puertas de finalizar la legislatura sería algo como dejar morir el tema puesto que la ponencia moriría con la legislatura

merezca modificaciones actualizando la situación que se vivía ahora

y de los entes que trabajan en el campo de la violencia de género y por tanto este grupo se compromete a que si ustedes

propongan el comienzo de la próxima legislatura la construcción de esta ponencia desde luego ahí nos encontraremos porque creo que es un tema a reflexionar y los suficientemente importante como para no dejarlo morir porque en seis meses no da tiempo a hacer la reflexión que este tema merece nada más muchas gracias

y es que efectivamente no caben respuestas parciales ante una cuestión que requiere un enfoque integral que requiere una respuesta para poner verdaderamente en el foco en nuestra agenda política la erradicación de las violencias machistas como una prioridad política como un problema político de primer orden

diez años con una ley de igualdad que se ha caracterizado por el incumplimiento sistemático y esto hay que mencionarlo porque esta ley

múltiples violencias machistas que también aquí nosotras vivimos la ley de violencia de género del estado español también lleva once años es una ley que se ha quedado obsoleta es una ley que no se adapta ahora mismo a las necesidades que se tienen y que hay que hacer una revisión y esto es

sobre todo yo creo que es muy importante a la hora de referirnos a este tipo de cuestiones

hablar con sinceridad y hablar con sinceridad es establecer recursos para aquello que llevamos a cabo y claro

presupuestario del partido nacionalista vasco y el partido socialista treinta y cinco millónes de euros y no hay nada destinado a políticas de igualdad claro es ahí donde vemos que realmente

no se ve reflejada tampoco vemos ni siquiera en este pacto

seis millónes de euros para políticas de igualdad seis de un presupuesto

de euros es que yo creo que esto lo dice todo esta es la representación gráfica de lo que para el gobierno vasco representan las políticas de igualdad

seis míseros millónes de euros objetivamente yo creo que no y es poco serio si verdaderamente queremos avanzar y esta propuesta y le contesto a la señora lexuri

aprueben la enmienda parcial planteada por euskalerria bildu en materia presupuestaria

más que considerable para realizar una estrategia integral no solo en el ámbito de violencia machista en cuanto a la parte física sino de manera integral para erradicar

vamos a ver la honestidad de sus palabras que no se las lleve el viento porque señorías estamos aquí muy cómodos ustedes responsables políticos sin ruborizarse sin sentir vergüenza

como enfoque o como prioridad política la erradicación de las violencias machistas el veinticinco de noviembre pero en realidad yo voy a decir una cosa les importa

de la violencia estructural que es la que genera las violencias machistas porque no puede ser posible que para ustedes sea suficiente la fachada de un parlamento con un punto lila o una declaración institucional muy bonita

que se queda en el cajón y que sirve para que puedan ustedes dormir tranquilos para tapar y cubrir sus conciencias

días del año por favor no seamos cínicos no seamos cínicos si verdaderamente queremos ser honestos queremos hablar y queremos erradicar la violencia machista en todas sus magnitudes

vamos a hablar de recursos vamos a mostrar esa voluntad hay una propuesta encima de la mesa

tengan el valor de aprobar esta propuesta porque de lo contrario seguiremos viendo

de las violencias machistas y ese tránsito hacia la igualdad pasa por un enfoque integral que desde luego no es gestionar lo existente si desde luego queremos la igualdad y esa erradicación de la violencia estructural que genera todas las violencias tenemos que dar un tránsito bastante considerable que desde luego no pasa por declaraciones de intenciones o por parchear y hacer propuestas de mínimos

política que tiene que ser el problema número uno de nuestra agenda para erradicarlo si sería en ese caso si se daría esto nos tendrían
estaríamos plenamente con ustedes para avanzar pero por desgracia estamos ahora mismo en las antípodas eskerrik asko

la pregunta se la dirijo a usted usted duerme tranquila después de venir aquí a hacer el papelón su partido es el partido de la incoherencia según dónde gobierne hacemos una cosa o hacemos otra

porque me habla usted de la importancia de crear ponencias y resulta que la pasada legislatura ustedes gobernaban en la diputación foral de gipuzkoa y en la diputación foral de gipuzkoa también se pueden poner en marcha ponencias de hecho lo hicieron para el tema de la pobreza energética

ni para aprobar el segundo plan foral de igualdad dos mil trece dos mil veinte que abarcaba un espacio de tiempo importante como para crear esa ponencia

entonces no hizo falta en ese caso se confía plenamente

de los técnicos de igualdad y de los políticos a la hora elaborar y aprobar las políticas más adecuadas para abordar en materia de igualdad

que tenemos que abordar esto de un modo integral y demás o sea que a usted no le vale el plan específico que venimos a presentar o que se presentó en julio aquí pero luego resulta que en el ayuntamiento de iruña en mayo de este mismo año se presenta

sensibilización ciudadana por unas fiestas libres de agresiones sexistas esto es lo mismo que beldur barik guneak es lo mismo lo que puso el ayuntamiento de iruña en marcha las pasadas sanfermines y los datos cuáles son

el conjunto de policías ha recogido cuatro denuncias por tentativa de agresión sexual frente a las cinco contabilizadas en dos mil catorce y una de ella sabemos que fue

como fue una mujer una chica fue agredida en un baño en un bar durante la fiesta san fermín

le parece poco implementar este tipo de planes pero allá donde ustedes gobiernan es lo que ponen en practica

le parece interesante entonces si alguien piensa que por arte

esto va a desaparecer de raíz pues está muy equivocado no tenemos más que ver y analizar los últimos datos como ya se ha comentado

prospección sociológica del gobierno vasco sobre la violencia contra las mujeres en euskadi para ver

pero también es de justicia decir que los datos facilitados comprenden entre las fechas de enero a junio y de ahí que en julio se presentará y se pusiera en marcha

aun queda por analizar y evaluar los resultados en los municipios que implementaron el plan y comprobar si se ha logrado promover una actitud de empoderamiento en las chicas

pero démosle una oportunidad así como se ha hecho en iruña analicemos los resultados mejoremos si es preciso las actuaciones

sobre todo difusión y aunar fuerzas hablando de difusión

que cree que ha habido un crecimiento de denuncias de agresiones sexuales porque las mujeres ya no se callan ya no consienten tocamientos y los denuncian y ha llamado a no caer en el alarmismo y eso es bueno que las mujeres no se callen es bueno es el resultado de estas campañas de sensibilización

para todas las personas una sociedad que dé un paso más y además que mostrarse como la violencia hacia las mujeres

abogamos por una sociedad en la que las relaciones entre las personas se basen en el respeto la autonomía y la igualdad

que cada persona pueda dibujar su trayectoria vital sin la limitación que supone la desigualdad desde las instituciones debemos asumir nuestra responsabilidad social y política en la construcción de una sociedad

por el ejercicio personal y colectivo de revisar nuestros prejuicios roles y actitudes cotidianas horregatik guztiagatik konpromisoa hartzen dugu gure